asimismo insta a las instituciones que tenemos una responsabilidad crucial en su erradicación

para lograr su definitiva desaparición de tal modo que no se vuelva a producir ningún acto de violencia contra las mujeres y mucho menos asesinatos como el que ha costado la vida

para ello el parlamento vasco considera que es de vital importancia proteger mejor de lo que se hace hasta ahora a las y los menores de la violencia machista en tanto que ellos y ellas son también víctimas de este tipo de violencia

buenos días muchas gracias presidenta antes que nada tengo que decir que a nuestro grupo

comisión promotora de esta ilp hubiera tenido la posibilidad de presentarla y defenderla en este pleno somos partidarios de que

la comisión promotora pueda defenderla en pleno y pueda explicar sus argumentos y no solamente eso sino que incluso pueda estar también presente en la ponencia donde los diferentes grupos

y en la propia comisión donde se debaten las enmiendas de los grupos y donde finalmente se aprueba un dictamen nosotros esperamos que en próximas ocasiones

estudiando la modificación de la ley de iniciativa legislativa popular a iniciativa de upyd para que esto sea posible

partidarios de que esto pueda ser así en el futuro dicho esto vamos a votar a favor de la toma en consideración de la ilp

porque se trata de una iniciativa legislativa popular isiltasuna mesedez que surge de la ciudadanía

elaborarla y presentarla en este parlamento vamos a votar a favor de la toma en consideración porque queremos que este parlamento debata de manera seria y de manera rigurosa sobre el fracking

lo suficientemente relevante e importante que interesa a la ciudadanía y que por lo tanto merece nuestra atención esto además nos permitirá atender y conocer las explicaciones de distintos expertos sobre la materia para que quede claro desde el inicio estamos

en esta ilp es decir estamos en contra de prohibir la exploración investigación y explotación de hidrocarburos no convencionales en euskadi

inportantea delako eta jendeari interesatzen zaiolako quiero decir algunas cosas más adelantando algunos de los argumentos que expondré en el debate

de lo que se trata no es de prohibir totalmente esta técnica sino de tal y como propuso el parlamento europeo que el fracking se prohíba allí donde su uso implique un riesgo y real se trata por lo tanto de que la regulación sea exigente la actual ley nacional de evaluación de impacto ambiental de proyectos

insuficiente por ello presentamos el seis de marzo de dos mil trece una proposición no de ley en el congreso de los diputados y en la que señalábamos algunas cosas como las siguientes el coste de la energía es uno de los factores fundamentales de la competitividad económica con repercusiones directas sobre la economía del país y el empleo nuestra dependencia energética hace imprescindible la exploración investigación y valoración realista recursos en hidrocarburos y la viabilidad técnica económica y medioambiental de su explotación tanto de los recursos convencionales como de los no convencionales tales como

en capas de carbón organismos independientes internacionales advierten de que las técnicas de fracturación hidráulica masiva pueden producir daños medioambientales severos si no se realizan con suficientes garantías preventivas sin embargo la solución

de sus posibilidades y consecuencias sino establecer criterios legales rigurosos para autorizar la exploración y explotación con un daño medioambiental y reparable no existen fuentes de energía que no tengan algún tipo de impacto medioambiental negativo incluidas las fuentes energéticas conocidas como renovables por lo que la misión

coste impacto medioambiental y sostenibilidad regulando y evaluando constantemente las condiciones y requisitos de investigación exploración y en su caso

de ahí aquella iniciativa de upyd planteada para responder de modo positivo a la inquietud ciudadana y dar las garantías adecuadas

de esta ilp si analizamos lo sucedido con otras iniciativas similares adoptadas en otras comunidades autónomas donde se ha prohibido de manera absoluta e incondicionada el empleo del fracking concluimos que esta iniciativa si se aprobara tal y como está sería inconstitucional contradice lo dispuesto

de hidrocarburos porque tal y como señala sentencia del tribunal constitucional la prohibición impuesta por el artículo uno de la ley impugnada la de cantabria

en materia ambiental y por otro lado la prohibición

y explotación de hidrocarburos no puede decidirse por una comunidad autónoma en todo caso como decía al principio queremos que se debata

mitos e infundios por lo que votaremos a favor de la toma en consideración y plantearemos enmiendas para corregirla a fondo en la línea de lo que he

gracias señora presidenta buenos días lehendakari consejero consejera

de la iniciativa que tiene como título proposición de ley de medidas adicionales de protección medioambiental para la extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura

y de la mano de su comisión promotora decir que es conforme con lo que establece la ley de iniciativa legislativa popular

de este derecho en nuestra comunidad autónoma y que en su artículo cuatro regula el procedimiento a seguir para estas iniciativas la mesa del parlamento vasco en su reunión del cuatro de noviembre dos mil catorce acordó admitir a trámite dicha proposición de ley

nos encontramos hoy en el debate de toma en consideración que les anuncio que el grupo popular va a votar a favor de la toma en consideración de esta iniciativa legislativa popular entre los muchos derechos que reconoce la constitución a los ciudadanos españoles

del país en un sistema democrático son varias las formas que los ciudadanos pueden participar la más conocida y principal es el sufragio el voto cuando hay elecciones

pero no menos importantes la iniciativa legislativa popular es una de ellas y tiene como principal objetivo que los diferentes sectores de la sociedad puedan presentar

para su toma en consideración debate y si procede posible

se recoge un sentir de una parte de la sociedad vasca y se plantea un texto que desde el grupo popular y sin entrar a valorar el fondo entendemos debe ser tomada en consideración todos conocemos las diferentes iniciativas legislativas referentes a la fractura hidráulica aprobadas en otras comunidades autónomas

la rioja navarra cataluña y también conocemos la suerte que les afecta conocemos la legislación básica española y en base a esta

que el gobierno ha presentado uno a uno correlativos a sendas aprobaciones y el pleno del tribunal constitucional va estimando estos recursos también uno a uno

idéntico resultado no entra el tribunal constitucional en valorar si el empleo de determinada técnica es o no adecuada sino que declara la inconstitucionalidad de la norma porque invade la competencia exclusiva del estado porque

respetar la ordenación del sector energético y dentro de este el subsector gasístico es una competencia

del estado señorías en estos términos se basará las aportaciones que el grupo popular incorporará al debate en ponencia

nosotros entendemos que vamos a utilizar o intentaremos utilizar todos los medios y competencias que desde nuestra posición como comunidad autónoma podemos aplicar con el fin de incorporar un nivel más alto de protección del medio ambiente para la actividad de extracción de hidrocarburos no convencionales y la fractura hidráulica o fracking especialmente para aquellas zonas de especial

esta es la posición que el grupo popular va a tomar ante esta iniciativa legislativa popular eskerrik asko lópez de ocariz andrea

y la fractura hidráulica o fracking es lo que hemos venido reclamando regular desde el ámbito de nuestras competencias en la extracción de hidrocarburos

las garantías sanitarias medioambientales energéticas y jurídicas en torno a esta actividad y queremos que el resultado del trámite parlamentario que se inicia sea ese precisamente los socialistas no queremos debates de buenas intenciones queremos que lo que los firmantes de la ilp reclaman sea viable

sea el limbo sea una anulación por el constitucional que deje vía libre a quienes precisamente están impulsando proyectos económicos

lo que hacen y su alcance real porque sabemos que tenemos reservas de gas sabemos que necesitamos abordar estos recursos para ganar en autosuficiencia energética

pero no sabemos el alcance real no sabemos si las proyecciones energéticas a medio plazo son ciertas y no sabemos la incidencia a medio plazo en el medioambiente

en los que el fracking es una realidad a través de empresas que tienen también intereses en euskadi

e inversiones gigantescas apoyadas con recursos públicos que ni están dando los resultados estimados

euskadi es la única comunidad autónoma que apuesta por el fracking con dinero público a diferencia del resto de comunidades autónomas por eso queremos regular aquí y desde nuestras competencias

lo venimos diciendo en los últimos años aunque para nosotros ha sido difícil hacernos entender en nuestra postura ha sido difícil porque la decisión de analizar las posibilidades de esta técnica fue interpretada como un apoyo sin fisuras a estas explotaciones tendremos que volver a recordar que los socialistas no hemos defendido ningún acuerdo que avale estas explotaciones

de no conceder permisos si no había plenas garantías ambientales que siguen sin darse a día de hoy

las de los áridos en zonas protegidas como fue la cantera de zalloventa

después de que algunos quienes hoy tienen la potestad de conceder permisos de quienes son tan remisos a ofrecer información clara hicieran campaña en favor de una prohibición que hoy dicen es ilegal

hemos mostrado nuestras discrepancias con la base de este debate y apostar por una discusión racional entendemos ha sido torticeramente utilizado por otros pero nosotros

lo mismo que defendemos una necesaria ley de cambio climático también nos hemos mostrado exigentes en las cautelas ante el fracking

nuestra posición favorable a esta tramitación es la que expusimos hace un año cuando aprobamos la ley de conservación de la naturaleza y catorce meses después los socialistas vascos reiteramos

queremos datos técnicos de los pros y los contras de cada posible actividad extractiva incluida el fracking creemos

creemos que el debate ambiental debe ser paralelo al debate energético a nuestras necesidades que debemos afrontar entendemos sí o sí

pero que pueden esconder determinados intereses empresariales y mientras se produce ese debate no queremos permitir ninguna actividad de explotación

queremos seguridad en esta tramitación y queremos seguridad después del debate parlamentario conocen lo promotores nuestra discrepancia con los artículos tres y cuatro

que se lanzaron a la prohibición y hoy tienen sus normas suspendidas por falta de competencia y mientras resuelven esa situación legal

exploraciones de fracking nosotros entendemos que ese no es el camino

autónomas proponemos a los promotores una ley que blinde de tal forma la protección medio ambiental que es lo que está en nuestra manos para que en euskadi

proponemos que el resultado dé seguridad jurídica porque eso es lo que dará seguridad a los ciudadanos por tanto votaremos a favor de la toma en consideración de la iniciativa legislativa popular

bat se ha dicho en esta comunidad autónoma que había fracking para sesenta años sabiendo que no había ningún informe que avalara esas previsiones y se ha dicho había que inflar la burbuja

sabiendo que no existe previsión económica ninguna ni informe económico ninguno que avale esos datos hacéis previsiones de millónes de euros se hacen previsiones de millónes de euros

eso es inflar una burbuja se firman contratos con empresas que se dedican al fracking invirtiendo millónes de dinero público

ni para la sanidad ni para la educación pública se dedican a una burbuja contaminante
millones de euros para inflar la burbuja del gas pizarra eskerrik asko maeztu jauna denbora amaitu zaizu bai

y a la plataforma fracking ez bienvenidos al parlamento

eztabaida sustatzearen alde gaudela las persona los ciudadanos y ciudadanas que hoy habitan en euskadi son más de esos ciento treinta mil y precisamente porque todos

los grupos parlamentarios estamos en la obligación

de ahí que se tenga que formalizar una ponencia que debata la proposición de ley que hoy aceptamos a trámite para

intentar pactar un texto y es nuestra intención que pueda satisfacer a la totalidad

asistirá a la ponencia con ánimo constructivo no lo duden con ánimo de aportar ideas que generen consensos desde la perspectiva de conocer lo que por lo menos

de conocer las medidas cautelares tomadas por el tribunal constitucional ante otras leyes similares ya aprobadas no solo es nuestra responsabilidad

cualquier declaración de anticonstitucionalidad y eso ha ocurrido en algunas comunidades que dijeron taxativamente fracking ez nos dejaría más desprotegidos ante una práctica precisamente de la que pretendemos estar protegidos y salvaguardados

es la protección ambiental en el ámbito práctico y no desde ineficaces brindis al sol nuestro deseo es colaborar con una política energética

y con amplitud de miras alejadas de cortedades opositoras a todo tipo de generación energética incluidas las ambientalmente sostenible como

pero eso sí reconociendo que la técnica sobre la que trata esta proposición de ley cuenta con una muy superior oposición somos conscientes incluida gran parte de europa

onura izanda ere nuestro trabajo será propiciar acuerdos basados en la aceptación de mejoras tecnológicas y ambientales y en la no aceptación de tecnologías dañinas

ni para la salud así como en admitir con todas las cautelas que sean necesarias que el saber no ocupa lugar y por eso investigar lo que hay

hemos sabido dotarnos muy recientemente de un marco jurídico viable para la regulación de los impactos en los espacios naturales protegidos dotando a tal marco de realidad

priorizando sobre todo la conservación constándonos que ese marco está siendo hoy evitado por otras instituciones parlamentarias y gubernativas

fuimos enormemente criticados si fuimos capaces de aquello estamos convencidos de que para la nueva tarea sabremos estar a la altura

y sus discursos retóricos hemos venido a votar a favor de la tramitación de esta proposición de ley

y lo único que nos han venido a demostrar hoy es sobre todo a mí que estoy todavía convaleciente y tengo los pulmones hechos polvo que tienen muy buenos pulmones yo hubiera sido incapaz

e inflar ese globo en cualquier caso todo esto dicho a cuatro de diciembre festividad de santa bárbara

sí gracias presidenta lo cierto es que hemos debatido en bastantes ocasiones la situación de

de kutxabank en este parlamento durante los últimos

en cuatro ocasiones sobre la cuestión el día veintiuno de marzo de dos mil trece se debatió una proposición no de ley de eh bildu relativa a asegurar el apego de kutxabank al territorio el día dieciocho de abril se debatió una proposición no de ley

en kutxabank el diecinueve de diciembre de dos mil trece se debatió una moción de eh bildu relativa a asegurar la prioridad principal de kutxabank que consiste en el impulso de la economía real

otra proposición no de ley de eh bildu sobre la deriva del proyecto de las cajas vascas y kutxabank y hoy debatimos esta nueva moción con la que

lo cierto es que nos plantea dos cosas por un lado se propone que este parlamento inste al gobierno a que se muestre contrario a toda privatización de kutxabank

garantizar de este modo su control público y social y por otro lado propone que este parlamento inste a las cajas de ahorros a que adopten un compromiso

toda privatización de kutxabank con el compromiso manifiesto de que todas las acciones de kutxabank queden en manos de las tres cajas de ahorros sus actuales propietarias garantizando

público y social a partir de ahí por lo tanto el asunto de la privatización es decir la posibilidad de que socios privados entren en el accionariado de kutxabank podría ser legalmente ineludible en principio la ley obliga a que bbk kutxa y vital reduzcan su participación en el banco a solo

kutxa el treinta y dos y caja vital el once el señor mario fernández el propio lehendakari el partido nacionalista vasco

veían bien la entrada de capital privado sin embargo parece que esta posición se ha visto modificada al menos en parte en los últimos tiempos de hecho el cambio de posición nacionalista vasco y del gobierno vasco en relación a la entrada de capital privado es lo que está detrás de la dimisión del señor mario fernández y esto es ciertamente curioso y llamativo el hecho de que el cambio de la posición política de un determinado partido político haya tenido como consecuencia la dimisión

de la fusión de las cajas de ahorros que se rige por una normativa aprobada precisamente para corregir la politización existente

cosa que por lo tanto demuestra que la politización a día de hoy sigue siendo un hecho

bandera de la antiprivatización en estos últimos tiempos el gobierno de españa

a impulsar una legislación que terminase reduciendo las posiciones de las cajas de ahorro fundaciones bancarias hasta quedarse con una participación minoritaria en las entidades financieras así tenemos la ley veintiséis barra dos mil trece que impone potentes incentivos para que las fundaciones se desprendan de en concreto se establece que ninguna caja pueda tener más del cincuenta por ciento del capital de una entidad bancaria a finales de octubre el banco de españa concretó más el escenario

es decir con unidad de criterio en la toma de decisiones del banco con lo que deben bajar su participación conjunta a menos del cincuenta por ciento y la alternativa a ello es dotar un fondo de reservas de setecientos millónes lo cual las traería

kutxa y vital han presentado alegaciones no sabemos si estas alegaciones tendrán éxito al parecer parece que sí y parece que el banco de españa

como tres entidades diferentes es decir de manera autónoma lo que evitará tener que vender el cincuenta por ciento si finalmente fuera así solo bbk estaría obligada a reducir su participación

un fondo de reserva aproximado de trescientos millónes de euros en todo caso es obvio que la ley nacional y la normativa europea deben cumplirse y a partir de ahí kutxabank deberá tomar las decisiones que considere para alcanzar los objetivos que señalamos en la enmienda

básicamente defendemos lo que hemos venido defendiendo durante los últimos meses siempre que se ha debatido esta cuestión nosotros pensamos que es necesario que este parlamento diga qué cree indispensable garantizar una kutxabank

a día de hoy y ajena a los intereses de los partidos políticos

y profesionalizada bien gestionada y solvente todo ello para que pueda desarrollar y cumplir todos sus objetivos y funciones entre los que se encuentran

a las familias y a las empresas y por otro lado lógicamente lograr los mayores beneficios posibles cosa que evidentemente también fortalecería social en nuestra opinión es fundamental intereses de los partidos políticos se mantengan al margen de la gestión que lleve a cabo kutxabank en nuestra opinión es fundamental que el futuro de kutxabank de los equilibrios políticos en nuestra opinión es fundamental que el futuro de kutxabank lo decidan los mejores profesionales y que estos no se vean condicionados por los partidos políticos pensamos que es la mejor forma de garantizar su viabilidad su potencia y su solvencia es la mejor forma de asegurar la buena marcha de la entidad y de que se pueda fortalecer también social cuantos más beneficios más posibilidad de fortalecimiento

hacen falta personas con visión de futuro y capacidad de liderazgo

no fue la privatización lo que hundió las cajas de ahorros españolas sino precisamente su politización más concretamente la ocupación y la privatización de las cajas de ahorros pero por parte de los partidos políticos sin otro objetivo que ponerlas a su servicio lo que las llevó finalmente

las cajas de ahorros vascas estuvieron mejor gestionadas o al menos tuvieron mejores resultados pero lo cierto es que esa politización fue lo que llevó a la modificación

con esa politización a partir de ahí la desaparición de las cajas de ahorros o su conversión en fundaciones bancarias como es el caso en fin nosotros mantenemos nuestra enmienda de totalidad que creo que bien cuáles son los principios que nosotros defendemos en esta cuestión qué es lo que nosotros defendemos cuáles son nuestros principios en relación a este asunto cumplimiento de la legalidad profesionalización ausencia de injerencias políticas buena gestión y fortalecimiento

creo que es lo que más interesa defender al conjunto de la ciudadanía vasca y por esto

muchas gracias señora presidenta teníamos una enmienda pero la hemos retirado porque es evidente que es un debate que es falso no venimos a hablar ni de cuál tiene que ser el futuro de kutxabank ni nada parecido

y visto lo que hemos oído matizaré algunas cosas

hasta donde yo sé kutxabank es un banco privado y hasta donde yo sé las cajas de ahorros eran entidades privadas eran entidades privadas cuando el señor maneiro nos dice desde luego respecto a la normativa europea cuando el señor maneiro nos dice los mejores profesionales y este discurso

quién los elige en una democracia en un estado de derecho los ciudadanos votan los partidos que ganan están en las instituciones al final

que estamos de acuerdo con usted en que tienen que ser los mejores profesionales pero alguien los elige por lo tanto su discurso pues bueno queda muy bien

me puede explicar o decir qué caja de ahorros se ha privatizado en españa ninguna entonces vamos a ver de qué estamos hablando no solo no se han privatizado es que ahora resulta que nunca ha habido tantas públicas como hoy porque el frob ha tenido que intervenir el gobierno ha tenido que intervenir el bando de españa ha tenido que intervenir y ahora son públicas

durante un tiempo serán públicas porque supongo que todos estaremos de acuerdo en que cuanto antes los ciudadanos recuperemos el dinero que hemos invertido mejor para todos pero es que precisamente lo que ha ocurrido es lo contrario de la privatización entonces yo entiendo que aquí la gente venga con la matraca de la privatización pero como todo este debate es falso

me perdonarán que en fin que no entre en el debate

se están volviendo ustedes el grupo más conservador de europa es decir ustedes se han ido oponiendo a todos los pasos

para cuando llegamos aquí sean los mayores defensores de la situación actual

a esta situación se ha llegado en contra de sus votos en contra de su criterio durante todos

pero cuando se hacen las cosas resulta que son los mayores defensores lo cual tendría en fin yo creo que

llegamos aquí y dicen no ahora está fantástico ahora no hay que tocarlo pues a lo mejor ahora tampoco está tan fantástico

bildu nos dice que puede ser importante el tamaño para obtener beneficios

y mucho y mucho porque luego nos dicen es que nuestras empresas necesitan entidades financieras que las apoyen claro por qué se hizo la fusión porque había cajas que no podían financiar a nuestras empresas ninguna de las tres porque yo no sé si ustedes saben que existe límite de riesgos que una caja un banco

de un riesgo de crédito con una empresa que las empresas cuando necesitan más financiación y las cajas en su momento

hoy tiene ese límite y no lo puede sobrepasar y por lo tanto no puede financiar

claro que es importante en un banco o en una caja es muy importante

cosas o no poder hacerlas y además que dice y es importante para los beneficios hombre claro pero bueno su discurso también es contradictorio porque

entonces nunca han defendido los beneficios de kutxabank

será lo que plantean ustedes claro sin los beneficios evidentemente

para combatir la usura yo no sé si son conscientes de que a día de hoy el problema de kutxabank y de todos los bancos

que el negocio bancario prácticamente es cero yo no sé si son conscientes ustedes de que la obra social hoy que se hace en el país vasco pues casi en un porcentaje muy alto proviene de los beneficios de iberdrola y de las acciones que tiene kutxabank en iberdrola no sé si son conscientes

cuál es el beneficio real del negocio bancario hoy eso es lo que tendríamos que plantearnos hoy en este debate y qué banco

vasco queremos que sea cómo queremos que funcione queremos que funcione bien que tenga el tamaño suficiente que tenga beneficios o estamos jugando a tener como usted ha dicho no necesitamos algo grande sino algo pequeñito manejable que nos lo manejemos aquí

no es nuestro modelo y por eso vamos a votar en contra de su propuesta eskerrik asko damborenea jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den prieto jaunak dauka hitza

presidenta señorías el señor isasi nos propone hoy que

y a favor del control público del banco y también a favor de la función social que debiera de tener kutxabank y sus propietarias que son las cajas vascas la razón

usa para pedir este pronunciamiento es que no está muy seguro de las intenciones de mario fernández puesto que esto ya había sido abordado en una ocasión anterior no muy lejos en la fecha de esta que nos ocupa

optó por retirar su iniciativa los socialistas compartimos con quien quiera compartirlo que kutxabank debe seguir siendo

que kutxabank nos interesa porque nos interesan fundamentalmente tres cosas una su proximidad y su aportación

que su propia obra social por supuesto también nos interesa su aportación a la economía social y nos interesa su obra social la actividad que como empresa ejerce sobre el empleo y sobre la economía vasca no estamos hablando de una entidad menor en su tamaño en su volumen y en su aportación laboral y económica a la sociedad vasca normalmente se le pone mucho énfasis mucho interés siempre se ha hecho con las cajas con kutxabank en la obra social y la obra social es importante

de la política social que tiene que haber en las instituciones pero es evidente que el volumen el tamaño de lo que maneja en recursos

y el volumen de lo que significa en la aportación a la economía del propio país vasco es probablemente de una intensidad mucho mayor que el propio gasto y la propia función de obra social que deriva de lo que se pueda dedicar de sus beneficios actividad si kutxabank fuera mañana una entidad financiera si fuera caminando hacia una entidad financiera sin estos componentes y con un mayor parecido del que ya tiene al sistema financiero privado desde luego que nuestro interés por kutxabank y nuestra posición política al respecto variaría sustancialmente pero no creo que este es el momento no es que en este momento

pero creo que este no es el momento en el que está sucediendo esto sino en el que quizás pueda suceder y a esto es a lo que los partidos políticos las instituciones

y estamos trabajando también compartimos con quien quiera compartirlo que algunos planteamientos

como los más adecuados y además yo creo que para muestra un botón

fernández demuestra que esta preocupación por algunos de sus planteamientos no era solo una preocupación

que se había extendido y fruto de manifestaciones públicas contrapuestas y matizando algunos posicionamientos públicos del señor fernández han provocado entre otras cosas que mario fernández ya no sea

de kutxabank por tanto su cese inducido puede apuntar en este momento a que la transformación de

pueda hacerse con una sensibilidad social mayor aunque ciertamente esto está por ver y por eso es razonable que este debate sea un debate en el tiempo que se mantenga porque la alerta los problemas están encima de la mesa

se abordó este asunto también fue a iniciativa suya como he reflejado anteriormente

sobre este asunto nosotros quisimos hacerlo de hecho trabajamos una enmienda posición política que la suscribimos con el partido nacionalista vasco entonces nuestro grupo parlamentario junto con el grupo

política pero usted retiró aquella iniciativa y fue imposible que hubiera un pronunciamiento en esta cámara

el debate con este precedente de seriedad y de rigor con el que usted trató en aquel momento este asunto quedó bastante deteriorada que esta iniciativa suya y que esta voluntad suya

con una solución política que pueda plantear este parlamento y precisamente por ese antecedente que lo consideramos

muy impropio de un debate político parlamentario nosotros hemos considerado que no era necesario hacer una enmienda a su planteamiento

si ve que va a salir alguna cosa diferente a la de sus intenciones

su propuesta por lo tanto no estamos ante la necesidad de producir un acto administrativo consecuencia de su moción pero sí por supuesto un pronunciamiento político que esto es lo que estamos haciendo y por esto yo sí voy a marcar la posición del partido socialista en tres razones los socialistas sabemos que estamos en un proceso de transformación del sistema financiero y que está a debate cuál es la propiedad que pueden tener las cajas sobre sistema financiero cuál es su participación pública

sobre esto trabajamos a diario los socialistas con mucha intensidad y aunque sobre esto hay plazos nosotros consideramos que apurarlos

porque algunos datos que aparecen cada día semana tras semana apuntan márgenes interesantes para este futuro de transformación que yo creo que tenemos que tener en cuenta citaré alguno de ellos

del banco de kutxabank yo creo que es una razón que debe llevar a la reflexión al pensamiento y que debe de tener su incidencia en cómo hay que hacer la transformación las últimas declaraciones del presidente del banco de españa otras de las posibilidades y de los márgenes que se introduce las exigencias europeas no son estáticas no están tampoco al margen de cada realidad y la propiedad de las cajas vascas sobre kutxabank con un saldo de buena gestión y de buen hacer deben de pesar

de las condiciones de reestructuración financiera y en eso

ponemos el acento y en lo que estamos trabajando los socialistas la segunda razón es que

a las cajas intervenidas que a las que no lo han sido a las que están bien gestionadas que a las que están mal gestionadas no es justo y la política vasca y la política española al máximo nivel si es que están a favor de esta diferenciación y sobre esto se viene hablando

como he dicho al máximo nivel sobre esto tiene que haber pronunciamientos y posicionamientos

al máximo nivel del gobierno vasco y del gobierno de españa es decir si se quiere desde la política haciendo esa diferenciación entre cajas buenas y cajas malas haciendo esa diferenciación entre las intervenidas y las no intervenidas haciendo esa diferenciación entre las bien y mal gestionadas

una reestructuración financiera con sensibilidad social que esté matizada por esa sensibilidad social como ha existido hasta hoy y como nosotros

y solo vamos a defender el protagonismo y el control público en kutxabank su papel de proximidad en la economía pública y privada su cercanía con la economía social y su participación en la obra social si la transformación

abocados no estuviera en esos parámetros rechazaríamos esa transformación hace muy pocos días el presidente del banco de españa luis maría linde

privatizar nada y añadió que se puede atender cada caso y que no hay tanta rigidez sobre lo que se debe y se puede hacer es evidente que estas afirmaciones dibujan un margen que hay que explorar y que solo al final de este recorrido el momento para tomar decisiones de mayor calado pero lo que yo afirmo

en esta cámara es que la reestructuración de kutxabank y la participación de las cajas en kutxabank y lo que se tenga que introducir de nuevo en esa reestructuración es algo que está abierto es algo que la política tratar es algo que la política lo puede matizar es algo que si el gobierno vasco y el gobierno de españa se empeñan en ello y lo tratan con quién corresponda

o de otra que ha abierto márgenes para ello el propio banco central europeo y el propio banco de españa y que por lo tanto en estos momentos el afán el acento debiera de estar en preservar esa función pública en preservar esa función social y en hacer esta reestructuración

lo que ha sido algo que ha dado cierto éxito a la economía y a la función social en este país que es como está compuesto controlado y como está gobernado el sistema financiero vasco que parte de las cajas y del banco

la evolución del sistema financiero avocan a las entidades a procesos de concentración por razones de eficiencia

de solvencia y solidez financiera el aumento del coste de la deuda la reducción de sus plazos

y en general las importantes restricciones en la capacidad de financiación en los mercados son factores que confieren en la actualidad y para el futuro un mayor valor estratégico a la dimensión capacidad de gestión

alterar la situación de mercado de los últimos años al alterarse en los que las diferencias en las condiciones y costes de financiación entre entidades de diferentes escalas

mínimas a diferencia de lo que ahora nos toca vivir hay una fuerte concurrencia de demandantes de capital y mayores exigencias de capitalización por lo tanto una más débil generación interna de resultados

la confianza de los clientes y los mercados ya no depende solo de la eficacia eficiencia y solidez sino también de la dimensión la capacidad de gestión

y cuota de mercado de las entidades de crédito honek zuen sinadura jaso zuen

respeto a las decisiones que adopten las cajas en relación con el futuro de la entidad

y por otra parte responsabilidad en las facultades de supervisión y control que tiene atribuidas en materia financiera

kutxabanki no entendemos cuál es el origen y a qué se debe la obsesión que bildu tiene

perjudicando así a quienes tienen su ahorro en la entidad financiera eskerrik asko eskerrik asko gorospe

muchas gracias señora presidenta el que ha hablado desde el principio de más un banco y de la banca y tal la crisis de la banca

y de algunas cajas tampoco de todas de la mitad de las cajas o de la mitad del porcentaje del negocio de las cajas porque en fin la caixa tampoco ha tenido ningún problema que no somos los únicos

entre otras cosas porque la fusión tapó algunos y eso creo que también lo sabemos todos dice usted que el diputado general de álava dice que retorne a las fundadoras

es más para su información le diré que cuando se trajo aquí la legislatura pasada la reforma de ley de cajas

y que evidentemente las entidades fundadoras tenían que estar por qué porque nosotros siempre hemos tenido muy claro de quien eran las cajas de los que la fundaron

no era etéreo ahora otra cosa es que también si queremos olvidarnos nos olvidamos y cuando europa exige que no sean entidades públicas y que sean privadas se va bajando la participación de las entidades fundadoras que va dando mayor porcentaje en positores y en sindicatos para que al final tengan menos del cincuenta por ciento

fue así y luego además se dé entrada a otros municipios que ni fueron fundadores

salvo clientes entonces nosotros eso lo tenemos muy claro pero también tenemos muy claro una cosa

y no hace falta entonces el banco está para otras cosas para no desahuciar etcétera

no hace falta obtener beneficios esto es el debate o sí hace falta y además como en la obra social se hace en las fundaciones cajas llámele usted como quiera al final viene a ser lo mismo

beneficio y su rendimiento y lo que tiene que hacer es la obra social

invirtiendo parte en el banco y parte en otras cosas porque claro si al final el rendimiento de las acciones en kutxabank para las cajas

resulta que es el cero coma cinco pues hombre parece que hasta yo que sé hasta la compra de bonos rinde mucho más y da más beneficios para hacer obra social por ejemplo sería otro planteamiento

que privatiza se privatiza se privatiza aquí no se privatiza nada aquí

qué queremos y los que no lo tienen nada claro son ustedes claro sí es que se opusieron se han ido oponiendo a los pasos que se han tomado en los últimos

no estamos tan bien y hay que mejorar mucho y hay que hacer muchas cosas

pues oiga parte de ese tamaño se lo da cajasur además de beneficios a lo mejor más que otras de las tres cajas de este territorio

señor isasi para nosotros este no es un debate artificial podría poner aquí innumerables ejemplos de

este es un debate de fondo este es un debate importantísimo para la sociedad vasca de cómo se resuelva esta transformación de las fundaciones bancarias dependen cosas muy importantes para la sociedad vasca depende que haya un sistema financiera público que tenga una sensibilidad

sensibilidad en la obra social y una aportación fruto de esa sensibilidad en esos aspectos o depende

como por ejemplo puede ser el banco santander para lo cual al partido socialista kutxabank le daría exactamente igual y las cajas le darían exactamente igual y el riesgo de fondo que hay

no se hace con unos criterios públicos y con unos criterios sociales se pueda apoderar de esta realidad financiera económica y social el sistema privado con lo cual daría al traste lo que ha significado esto para la política y para la sociedad vasca y por eso a nosotros nos parece que este es un debate absolutamente de fondo y nos parece bien la alerta

el problema está en dónde ponemos el acento y si el acento lo ponemos en una especie

esa parte pública y efectivamente los caminos pueden ser distintos pueden ser no a gusto de todos pero los hay y yo he hecho una manifestación en esta tribuna diciendo que

ha hecho en estos días unas afirmaciones muy interesantes ha abierto márgenes ha dicho no hay porqué privatizar nada no es lo mismo las cajas intervenidas

no hay porqué interpretar de una forma estática y única cómo se plantea desde las condiciones de la unión europea esta reestructuración

y el gobierno de españa sabe más de lo que dice e incluso en algún momento yo afirmaría más de acuerdo de lo que en estos momentos aparecen otra cosa es si eso está en este momento en un punto muerto o no el gobierno vasco y el gobierno de españa saben que desde el trabajo político

de españa se puede encontrar una interpretación de la normativa europea para que esta reestructuración de fundaciones bancarias se haga respetando y preservando algo que ha funcionado aquí y que todo el mundo lo acepta y que para más muestra

más solvente de este país por lo tanto eso no se puede echar en saco roto

y por eso hay un planteamiento de que lo público lo político no tiene que estar mezclado con esto porque lo profesional parece que garantiza los aciertos y que está a salvaguarda de los excesos y de los abusos

la banca a nivel nacional y a nivel internacional para saber que lo privado no es garantía de nada y desde luego lo privado no tienen porqué albergar valores públicos ni valores sociales

valores privados valores de interés privado en una entidad financiera por lo tanto en fin

obviamente yo no lo comparto por eso lo que sí creo es que aquí lo que debiéramos de hacer es intentar ponernos de acuerdo no lo va a ser en su planteamiento

cómo empujamos para que esta reestructuración de las fundaciones bancarias se haga de acuerdo a un interés público a un interés político

para el conjunto de la sociedad valores de redistribución de riqueza valores de atención social valores de cercanía a la economía local valores de cercanía a la economía pública valores de cercanía hacia la economía social todo esto está en lo que han sido

y lo que tuviera que ser como propietarias de kutxabank el propio kutxabank esta es la realidad este es el histórico del sistema financiero que ya hunde sus raíces

esto es lo que hay que intentar preservar y yo creo que ahí es donde tenemos que buscar un punto de encuentro efectivamente este es un debate de calado es un debate importantísimo

tiene la política vasca el que tiene más volumen en la política vasca y

creo que es bueno prestarle esta atención pero creo que también es bueno que pasemos a encontrar un punto de encuentro entre los principales partidos políticos para que podamos empujar que esta restructuración de las fundaciones bancarias no se haga hacia un privatización pura y dura como algunos apuntan sino que se haga

exigencias europeas pero preservando lo público

aipatzen ezer por qué no hacen uso ustedes de sus responsabilidades por qué ustedes no hacen suyos la capacidad que pueden tener

dónde está la responsabilidad de bildu por qué deberes a todos

sillas vacantes esa es la imagen que vais a querer esa es la responsabilidad

porque bildu no asume su responsabilidad donde le toca porque bildu podría tener capacidad de decir no se vende ni una acción y no y no por qué para que siga siendo objeto de conflicto para que siga siendo objeto de controversia para que siga siendo algo con lo que reprochar al pnv y una piedra arrojadiza hacía el pnv y eso solo tiene un nombre falta de responsabilidad porque quien es honesto

realmente si pone deberes tiene que poner deberes a todos a todos empezando por uno mismo cuando es quien ha hecho dejación de la responsabilidades que tenía

con esta voz que tengo casi no puedo ni hablar en fin

hace quince días el tema de las viviendas de benta berri es un tema que viene de lejos que viene desde hace mucho tiempo y si hay algo que en este asunto no ha habido desde luego ha sido ni premura ni precipitación

adjudicaciones de esas viviendas de protección oficial en benta berri y quince años de continuas frustraciones para los vecinos y de soluciones

cuando comienza este asunto cuando se hace una operación con los terrenos

las viviendas terrenos que pertenecían al ayuntamiento de san sebastián al gobierno vasco y una parte muy mínima al estado

y se le cede al gobierno vasco las parcelas es más dichas parcelas son publicitadas por parte del gobierno vasco como un gran logro

del gobierno vasco al folleto que se entregó en ese momento pueden verlo muy claro aquí

y platillo para apuntarse los logros sí estaba después para solucionar los problemas que han ido surgiendo desaparecen total y absolutamente es en el años mil novecientos noventa y dos como decía cuando se convoca un concurso de propuestas concurso que después al años siguiente de resuelve y en mil novecientos noventa y cuatro es cuando se acuerda adjudicar a una ute formada por metrovacesa y vallehermoso

se establece que el alquiler tendrá un plazo de duración de doce años y como decía ya en estos primero momentos a pesar de anunciarse bombo y platillo por parte del gobierno vasco que era un logro de él el gobierno vasco ya desaparece ya en esos primeros momentos desaparece

cuáles son los primeros problemas los primeros problemas es que en el borrador aparecía claramente ese derecho a adquisición preferente

pero se establece claramente que tendrán ese derecho pero eso sí cuando luego tienen que firmar los contratos ese derecho ha desaparecido de los contratos

esa opción pues porque les dan dos días para firmar el contrato y cuando a una persona que necesita una vivienda se le dice o firmas o te quedas sin casa porque hay más gente detrás de ti pues al final acaba firmando el contrato pero yo creo que ya

presente el gobierno vasco para que se hiciera realidad un compromiso que aparecía en el folleto porque lo demás

y tienen razones para sentirse engañados desde ese primer momento

que han gestionado vivienda contactos que

no han aportado una solución definitiva a pesar de como digo de que es una asociación muy activa es una asociación en la que los vecinos se han movido mucho porque

bloque entero de documentación que me la han aportado los vecinos porque el otro día el señor consejero dijo aquí que este grupo

porque no podía ser de otra manera porque el gobierno vasco me había aportado la documentación

a una solicitud de información que se hizo a principio casi de esta legislatura por parte de nuestro portavoz

en lo que hace el gobierno vasco es decir en resumen que no tiene nada que hacer y como décimos ya desde ese momento

no se materializa e incertidumbre porque no se han ido

surgiendo terminan las dos legislaturas del consejero madrazo y la solución a los problemas que ya entonces existían no se dan es verdad que como dije el otro día hubo una propuesta de resolución de recuperar las viviendas para el interés público

la catalogación como la calificación de vivienda de protección pública permanente pero esa solución cambia el gobierno y finalmente se le dice que no es posible es el dos mil diez cuando a propuesta de este grupo el gobierno vasco tras conversaciones y negociaciones con la ute obtuvo el compromiso

con la ute el compromiso de un nuevo sistema de prórrogas por cinco años y a partir de ese momento prórrogas de un año pero la realidad es que los vecinos que permanecen en las viviendas desde el principio y aquellos que se han ido incorporando porque es verdad que algunos abandonaron estas viviendas no saben muy bien lo que va a ocurrir en los próximos años y padecen una indefinición

alquileres rentas mensuales que son superiores a las de otras viviendas de protección oficial y además como dije

hay familias que sus hijos se han hecho mayores y han abandonado la vivienda y por tanto necesitarían en este momento una vivienda más pequeña por la que pagar menos renta y al revés familias que se han ido haciendo más grandes que han visto aumentados sus miembros

la vivienda se le ha quedado pequeña y no pueden hacer permutas por ello una de las solicitudes que hacían era que la propia ute les permitiera hacer permutas en esa misma promoción y algunos

lo que hace es que en seis meses no tiene que tener una vivienda para poder optar a una por lo tanto soluciones siguen

yo lo dije el otro día aquí se lo dije al señor consejero hemos intentado mantenerlo al margen del debate político se dijo el otro día aquí que

no se sabía para qué se mantenían contactos con el gobierno si luego no servían para nada

que yo me había reunido con la viceconsejería de vivienda para intentar solucionar este tema es que es más cuando yo hablo con los vecinos

una solución porque no es cuestión de debatir políticamente este tema es cuestión de encontrar una solución a los vecinos lo que pasa que es que el tiempo pasa

y no hay ninguna solución ni visos de que vaya a haberla y yo creo que es verdad que por encima

hay que traer aquí al debate político en esta es verdad y yo puedo compartir lo que se ha dicho aquí que aquí hay dos partes una relación entre los vecinos y entre la empresa pero lo que no comparto es que el gobierno vasco no pueda hacer nada

en esa relación porque se han dado otros supuestos en lo que a pesar de existir una relación privada cuando hay intereses públicos y cuando se tratan de viviendas de protección

ha habido intervenciones pero no solamente en estos casos en otras instituciones se dan

de lo que se trata es de tener voluntad para que esa mediación se da y para que esa mediación tenga sus frutos

la interpelación que había habido una reunión con la ute

por lo que supimos aquí en la interpelación el otro día tampoco parece que se haya avanzado mucho en esa reunión no ha habido reunión con los vecinos y yo espero

cuáles son las peticiones de los vecinos las necesidades de los vecinos y ver cuáles son las aportaciones de la empresa e intentar mediar

toque a su fin para que esas permutas que están solicitando se puedan solicitar y para que esa dificultad que en este momento tienen para apuntarse se pueda solucionar porque es cierto aquí lo que se dijo por parte del señor consejero y es la enmienda que se ha presentado por parte del partido nacionalista vasco es que se cumpla la ley hombre solo faltaba

dado a proponer desobediencias civiles ni desobediencias legales no pero las leyes se pueden cambiar

se pueden hacer modificaciones en esa ley para solucionar esos problemas

y en otros temas y eso es lo que nosotros planteamos si se iba a hacer por parte del gobierno y vimos que no que por parte

del gobierno vasco no existe voluntad más allá de vigilar el cumplimiento de la ley que por otra parte es

pero nosotros como digo sí creemos que se puede hacer más sí creemos que se pueden solucionar los problemas sí creemos que se puede escuchando a las dos partes

sino con todos por lo menos con gran parte de la incertidumbre de los problemas que tienen estos vecinos y por eso presentamos la moción

a una enmienda de transacción con el partido socialista y con upyd le quiero agradecer desde aquí al señor maneiro y al señor itxaso la verdad es que

del grupo bildu porque es verdad que su política de vivienda pasa por exclusivamente el alquiler

cuando se haya posibilidad de venta de viviendas de protección oficial las adquiera el gobierno vasco para destinarlas al alquiler

que si eso sucediese se estaría en parte frustrando los ofrecimientos que en su momento se hicieron a los vecinos es decir que si salían a la venta ellos lo iban a poder comprar aunque es cierto que en este momento y tal y como está la situación muchos de ellos

es que eso es lo que quieren y que van a poder realizar esas permutas y que van a poder en su caso si tienen más dificultades poder acceder a etxebide por eso finalmente y con relación a la enmienda

que se cumpla la ley pero creo que eso se da por sobreentendido y por eso hemos llegado a una

instamos es al gobierno vasco a través de la viceconsejería de vivienda a mantener esos encuentros entre los inquilinos de las viviendas de protección oficial de benta berri y la ute a valorar sus demandas y planteamientos y a mediar entre ellos a fin de encontrar una solución conjunta y definitiva a la situación de indefiniciones e incertidumbre actual el segundo punto lo que se insta

que se pongan encima de la mesa a la ute es la posibilidad de que los inquilinos puedan realizar permutas entre ellos cuando hay un cambio de necesidades o circunstancias posibilidad que en este momento no tienen y en último lugar instar al gobierno vasco a modificar la orden que regula la inscripción como demandantes en etxebide con el fin de que puedan acceder a este registro

u otros arrendatarios de vivienda pública que se encuentren en situaciones similares siempre y cuando obviamente cumplan los requisitos

contemplados en la normativa en vigor como decíamos creemos que el gobierno que el departamento de vivienda puede hacer mucho en este asunto que puede y debe implicarse más porque más de quinientos familias así lo están demandando y necesitando y por ello

es una buena oportunidad para comprobar para qué sirve la política en el día de hoy

este es un asunto que hunde sus raíces en el tiempo que tiene un pecado original que ha dado lugar a una situación que se ha prolongado en el tiempo que concierne a una serie de vecinos del barrio de benta berri que quieren obtener algún tipo de certidumbre sobre el futuro

y por lo tanto es oportuno un asunto de este tipo para ver hasta dónde puede llegar la política es verdad

por límites y contornos muy precisos que a veces no permiten más allá del voluntarismo

diques de contención que no permiten tomar decisiones sin embargo nosotros creemos que este es un asunto clásico

actual es posible hacer cosas es posible perfectamente ponerse de acuerdo en ver la posibilidad de que las pretensiones de estos vecinos

tienen alguna posibilidad de ser atendidas yo no digo que se vaya a encontrar soluciones pero ya constituye todo un comportamiento ver si realmente hay voluntad o no hay voluntad claro a la vista de las diferentes exposiciones que se hacen que quedan recogidas en las enmiendas es de lo que nosotros vamos a hablar porque el relato ya se ha hecho no vamos a entrar en el relato

como pasa casi siempre ocasión para

quién tuvo más culpa o quién tuvo menos lo cierto es que hay un pecado original que probablemente tiene que ver con el hecho de que en aquel momento de fuerte expansión inmobiliaria y urbanística se ponían en marcha

difícil de las cosas por lo tanto empezaré por decir que el gobierno y el grupo nacionalista que lo sustenta

faltaría más esto es una tautología no vamos a ir nosotros tampoco en contra de lo que son

las normas ni vamos a pretender ni mucho menos buscar aplicaciones singulares de derechos

claro la cuestión sería saber el gobierno estaría dispuesto realmente a activarse y a ver porque reuniones ha habido muchas efectivamente ya se ha dicho entre la ute benta berri y gobierno vasco

se podrán hablar las cosas yo no digo que de ahí vayan a resultar finalmente

proponer cuestiones y proponer fórmulas entonces nos parece que en principio el planteamiento general que hace el grupo nacionalista

no vamos a hacer nada nosotros creemos que hay que hacer algo aunque no dé resultados pero que hay que hacer cosas luego respecto de la

nosotros no estamos en contra de ninguno de los puntos el hecho de que

estaríamos de acuerdo naturalmente que sí de hecho está en derecho de superficie es decir la vocación final de ese suelo es revertir al dominio público por lo tanto nos parecería bien

que eso señora beitialarrangoitia ahora no disipa las dudas ni disipa las inquietudes que plantean el colectivo de ciudadanos concernido en cuanto al segundo punto también

que esta promoción tiene el baremo más alto el baremo más alto es decir se están pagando rentas de más de setecientos euros

lo cual no sé si eso sería aplicable a las familias más necesitadas es decir aquí se está aplicando los criterios de capacidades socioeconómicas se están pagando las rentas en función de sus capacidades y lo que nosotros defendemos es que efectivamente esto es así

visto que la empresa la ute benta berri ha dicho que efectivamente su vocación y su voluntad es la de mantener en el alquiler no es posible establecer

sigan conservando las condiciones y manteniendo los requisitos de acceso a estas viviendas de vpo en esta relación contractual privada mientras siga manteniendo

podrán seguir en el alquiler y se les da garantía de que efectivamente eso va a poder ser así porque claro hay un momento en el que los contratos se van a hacer año tras año y a propósito de lo de etxebide

antes de la finalización del contrato pero es que a partir de ahora estos ocupantes pueden encontrarse con que con recibir una carta un mes antes del vencimiento del contrato

tampoco le sirve de mucho porque en el último mes se pueden encontrar con un aviso de que por lo tanto nosotros creemos que

se plantea la posibilidad de buscar que esa calificación que es provisional

la posibilidad de prolongar la calificación de llevarla al carácter permanente que debe de ser la vocación de las políticas de vivienda al menos nosotros estamos en esa tesis

nosotros en nuestra enmienda no lo poníamos porque a la vista de lo que era la iniciativa original pues me creaba también un poco la dificultad de entender cómo conciliar eso en una relación contractual de carácter privado pero es verdad

intervenida porque esos contratos se visan en el gobierno vasco y entonces también tratando de alcanzar mayor conocimiento de la problemática tuve ocasión

representan a este colectivo y me explicaron por qué planteaban el tema de la permuta y efectivamente yo no había reparado nunca en una cuestión de ese tipo

son cosas que surgen a partir de un caso pero que como no caben aplicaciones singulares había que interpretarlo

con vocación de carácter general y claro el tema de las permutas resultaba interesante porque lo que dicen estos señores

se ha creado también una cierta cohesión en el barrio se ha creado un cierto ambiente de barrio hay gente que

identificado con el lugar después de ya bastantes años y por lo tanto el hecho de tener que salir de ese barrio por necesidades que han ido cambiando pues

y a mí me pareció en ese momento que era una reflexión interesante para

se da vida a los barrios cuando hay personas que llevan viviendo durante años y años y se va creando una suerte de vecindad

por qué no buscar fórmulas que permitan obviamente siempre en el bien entendido de que se respeta la legalidad vigente es decir una bolsa por la cual si una persona queda sola y su casa es excesiva

las condiciones socioeconómicas que les es exigibles por qué no hacerlo en esta y en otras promociones es decir para que

esa idiosincrasia que se crea en los barrios pues tenga una razón de ser a mí me ha pareció un argumento

y por eso no aparecía en nuestra enmienda inicial pero lo hemos suscrito sin mayor dificultad bueno por todas estas razones y muchas más

hay que tratar de buscar alguna solución no digo que sea fácil no digo que la solución esté a la vuelta

pero lo que sí décimos es que la política tiene que servir sobre todo para tratar de buscar esas soluciones y como diría alguno

este colectivo merece que los poderes públicos muestren claramente interés por buscar una solución a las pretensiones que mantienen nada más y muchas gracias eskerrik asko

muchos de los argumentos que han expuesto los distintos portavoces incluso algunos de los argumentos que se han expuesto desde el grupo que finalmente no firma esta transaccional

compartimos son todos ellos argumentos muy interesantes y que merecen una reflexión y que deberán ser discutidos en el futuro también en el marco de esa ley de vivienda que entre todos estamos intentando que llegue a buen puerto también me gustaría decir que

hoy en general de la política de vivienda que debe impulsar el gobierno vasco y que tampoco es este digamos un debate monográfico sobre vivienda pública

por una política de vivienda pública exclusivamente en alquiler adaptada a las necesidades de los ciudadanos revisable temporalmente y pensada nuevos recursos empezaría diciendo esto y todo ello para cumplir el mandato constitucional del derecho a una vivienda digna pero ya digo que este no es un debate

concreto de un caso específico estamos hablando de las viviendas de benta berri y la problemática existente entre los vecinos

los hechos que se han venido sucediendo en los últimos tiempos el propio consejero le daba la razón a la señora llanos en relación a los hechos descritos en aquella

y compartimos también el relato más allá de que pueda haber discrepancias sobre quiénes son los responsables o qué es lo que se hizo mal en su momento en todo caso los hechos los compartimos el tema es que a día de hoy existe una problemática

benta berri consideran que tienen una serie de problemas que podrían ser resueltos o que al menos podrían intentarse resolverse y que el gobierno vasco algo puede aportar en la posible solución de esa serie de problemas ya digo que no es fácil pero creo que el gobierno vasco si tuviera voluntad política algo podría hacer para resolver esos problemas planteados por los vecinos y esos problemas

están por un lado el tema de los alquileres altos efectivamente hay familias que están pagando ochocientos

de alquiler cosa que parece excesivo ellos ven también como problema las incertidumbres que padecen en relación a su futuro la indefinición incertidumbres que no lo olvidemos existen como consecuencia de determinadas promesas que se les hicieron en el pasado y en este punto tengo que decir que efectivamente estoy de acuerdo con el portavoz socialista cuando plantea que podría plantearse que mientras cumplan los requisitos se les asegure el mantenimiento del alquiler me parece una propuesta perfectamente razonable por lo tanto hay una serie de problemas

en relación a su futuro y también que

no adaptados en algunos casos a las necesidades de los inquilinos es decir algunas viviendas resulta que son

la familia necesita y otras son demasiado pequeñas y por otro lado y finalmente que solo pueden registrarse en el mismo régimen o en el de compra y durante seis meses anteriores a la finalización

los vecinos de benta berri y a partir de ahí intentamos plantear unas posibles soluciones

a esas reivindicaciones que realizan los vecinos o al menos aparte de esas reivindicaciones que realizan los vecinos y nosotros lo que décimos es que al menos

es la atención por parte del gobierno la posibilidad de que al menos el gobierno les escuche les atienda y escuche al menos sus

y el gobierno también dice que se ha reunido con los vecinos no sé si es exactamente así pero en todo caso sería interesante creo yo que el gobierno pudiera reunirse con los vecinos para al menos trasladarles cierta tranquilidad en relación

que nada puede hacer pero creo que al menos esa atención sí que lo merecen plantean también la posibilidad de llevar a cabo permutas entre los vecinos tal como planteaba la moción nosotros también lo vemos por eso hemos firmado esta transaccional y planteamos también que se les permita acceder al registro de

que no son excesivamente imposibles de cumplirse creo que son bastante razonables y creo que el gobierno vasco algo podría hacer el gobierno vasco dijo dice y recuerda que estamos hablando de una promoción privada y en consecuencia la relación que se produce entre los inquilinos y la empresa es una relación jurídica

y la única intervención del gobierno sería verificar que quienes acceden a esas viviendas cumplen los requisitos de acceso determinados en la normativa sobre vpo

el gobierno sí que puede hacer o intentar hacer algo para solucionar algunos

proponemos ni que se salte la legalidad ni proponemos cosas imposibles de cumplir pensamos que planteamos soluciones

bastante razonable creo que no es mucho pedir lo que proponemos en esa enmienda de transacción al fin y al cabo lo que proponemos es que este parlamento inste al gobierno

valorar sus demandas y planteamientos y mediar entre ellos a fin de encontrar una solución conjunta y definitiva a la situación de indefinición e incertidumbre actual

de que los inquilinos puedan realizar permutas entre ellos cuando hay un cambio de necesidades o circunstancias y

los inquilinos de las citadas viviendas de benta berri u otros arrendatarios de vivienda pública en situaciones

que lleve a cabo la modificación de esta orden el objetivo tal como se ha dicho y creo que es lo importante de esta moción y de este debate es dar una respuesta a los ciudadanos afectados por un problema específico y concreto pero que para ellos es extraordinariamente grave por lo menos intentarlo sin que ello tampoco suponga ningún trato de favor para nadie creo que

creo que el gobierno si tuviera voluntad puede hacerse podría intentarlo y por lo tanto nosotros votamos después de firmarla esa enmienda de transacción gracias